gracias señora presidenta buenos días a todos miembros del gobierno señorías en estas semanas de acelerada tramitación de esta proposición de ley hemos puesto el acento en una cuestión que para vox es nuclear la manifiesta inconstitucionalidad del texto planteado hemos criticado también la fórmula elegida para su tramitación urgente la invasión competencial que pretende ese incomprensible

niveles de riesgo y amenaza pero hoy lo que más llama la atención es que ustedes vayan a aplaudir la aprobación de una ley innecesaria como reconocen sus propios promotores

hoy ustedes van a aprobar el uso obligatorio de mascarillas hasta en la terraza de su casa justo el mismo día en el que el gobierno español nos va a liberar de ellas en espacios públicos en las calles en las playas en el monte qué van a hacer ustedes una pataleta como la última del señor fernández porque y ustedes lo saben bien

miles las personas que no estaremos dispuestas a dar por buenas estas imposiciones además este parlamento va a aprobar por la vía de urgencia una ley que llega mal y tarde que ustedes pretenden aplicar cuando el nivel de positivos por cada cien mil habitantes decrece a buen ritmo hacia los cincuenta

cuando empezamos a ver la inmunidad de grupo al alcance de la mano o debería decir de rebaño ese término que se ajusta mejor a la opinión que los partidos de gobierno tienen de la ciudadanía en comisión nos explicaron a regañadientes que quizás ahora no pero que esta ley puede servir para futuras pandemias

y en cualquier caso estar ligada al contacto social o a la difusión de aerosoles

y vuelvo al principio a la inconstitucionalidad de la ley este gobierno y los partidos que lo sustentan pretenden arrogarse competencias que no tienen

obligaciones que dependen de otros marcos legales y de otros órganos cierto que ahora incorporan la enmienda de la izquierda en el sentido de que la restricción de dichos derechos fundamentales

absolutamente para nada y antes de terminar solo un par de apuntes acerca de las enmiendas que mantenemos aun sabiendo que van a ser rechazadas

en españa como en la unión europea y siguiendo los dictados de la oms los niveles de riesgo son diferentes a los que ustedes pretenden imponernos con su ley los suyos son confusos por diferentes y por enrevesados la participación de expertos con prestigio y sin carné de partido ha de exigirse a los gestores

consideramos pues que esta ley es inconstitucional e innecesaria pero como no hay duda de que ustedes van a aprobarla con la complicidad de la izquierda

por supuesto en un ejercicio de responsabilidad muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

madrilen ere elkarrekin hoy como decía se aprueba una ley importante se supone que se aprueba una ley importante

de la pandemia pero tenemos que decir que su eficacia es cuestionable y su aplicación puede ser además inexistente viendo el escenario

actualmente decía que su eficacia es cuestionable por varias cuestiones se tratan de establecer limitaciones de derechos fundamentales

que ninguna comunidad autónoma puede limitarlos sin el paraguas normativo de un estado de alarma se incide en aspectos

pública que debería ser el soporte de las previsiones y contenidos de una ley de estas características y también en un artículo en concreto

enmiendas mejor dicho de corregir se trata de burlar el control judicial de las medidas en esta ley previstas por lo tanto como decía su eficacia es más que cuestionable su aplicación va a ser también inexistente

y a las declaraciones del propio lehendakari el otro día cuando señalaba que euskadi va a salir o puede salir próximamente de la situación del estado de emergencia

las medidas que se contemplan solo se pueden aplicar en el marco de esta situación

para nada decía que llega tarde y llega tarde porque se registró como todos

meses en esta cámara los trámites han sido absolutamente acelerados

se desarrolló en un día esta proposición de ley se ha tramitado por el trámite de urgencia y hombre una ley de estas características y de la envergadura de lo que

informes preceptivos informes que hubieran sido muy valiosos

porque no hubiera pasado el corte de algunos de esos informes la duda queda ahí

como una proposición de ley con muchas deficiencias tanto en el plano formal como en que hemos tratado de subsanar a través de ochenta y ocho enmiendas de las cuales los grupos proponentes nos han apoyado quince enmiendas agradezco y desde este grupo agradecemos la aceptación de estas quince enmiendas por parte de los grupos que apoyan al gobierno que van a contribuir sin duda a mejorar el texto en los aspectos formales no en el contenido porque los grupos que apoyan al gobierno promotores

no han querido establecer un diálogo o no se ha establecido un debate de fondo mejor dicho sobre el contenido de las propuestas que presentaba

nosotros a través de nuestras enmiendas por una parte tratamos de clarificar el tema competencial las restricciones de derechos fundamentales solo se pueden producir bajo el paraguas del estado de alarma si se pretende que tengan un carácter general

de las pautas marcadas por la propia jurisprudencia del tribunal supremo como recientemente lo ha señalado

si se acredita su carácter imprescindible y acotando de modo preciso el alcance personal territorial y temporal

el control judicial de las medidas que se ha tratado de laminar además en una previsión concreta en un artículo y por lo tanto eliminamos porque obviamente todas las medidas como no podía ser de otra forma

administrativa configuramos un verdadero labi un labi de expertos y no un labi político que a nuestro entender es lo que está ahora como está ahora conformado el

técnico y el labi político obviamente

proponemos también la realización de una evaluación externa de la pandemia esta fue una cuestión que

de las comparecencias recogemos también la situación del covid persistente garantizando un diagnóstico precoz y un adecuado seguimiento de esos pacientes tratamos también de garantizar una reserva estratégica de productos sanitarios esto ya sabemos que se hace

en esta ley expresamente queremos contar o reforzar también aquellos órganos con los que

como son las unidades de vigilancia epidemiológica el consejo asesor de enfermedades infecciosas o el consejo asesor de vacunas creamos también la figura

sanitaria y reforzamos todos aquellos aspectos

para para nosotros y para muchos profesionales y los propios expertos han podido resultar insuficientes

la atención primaria como ha sido la salud mental como ha sido la red de rastreo como ha sido el tema de los laboratorios en algún momento como ha sido todo lo que tiene que ver

residencias flexibilizamos también el régimen de visitas las salidas de las personas mayores con las cautelas precisas pero teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el confinamiento y la situación de

creemos que en este ámbito concreto hay que flexibilizar de alguna forma las previsiones contenidas

también hacemos una referencia que nos parece en este momento muy importante a todo lo que tiene que ser protocolos efectivos incluso ayudas concretas para

viendo que vamos a ir a una desescalada cada vez progresiva si el escenario lo permite que parece que es así en donde se vaya a interactuar mucho en los

cerrados y por otra parte dos cosas más reforzamos todos aquellos aspectos que tienen que ver con la información creemos que a lo largo también de todos estos

año la información no ha sido suficientemente clara

en muchas ocasiones con criterios contradictorios y cambiantes y en ese sentido pues hay que hacer un mayor esfuerzo y es algo que también contemplamos en una enmienda con la creación de un artículo también específico al igual que campañas de sensibilización

dirigidas a los colectivos más vulnerables y en estos momentos a los jóvenes que también es uno de los colectivos que más está interactuando y quiero acabar con una referencia a la hostelería que es uno de los colectivos de los sectores

que más han sufrido muchas de las medidas restrictivas que se han aplicado

las medidas de este plan se trasladan a este texto legal y quiero decir esto porque para nosotros

limitaciones y que afectaran también a la hostelería creemos que muchas de ellas no han estado justificadas

no se ha demostrado claramente la vinculación entre el incremento de contagios teniendo además las tasas de incidencia más elevadas

de todas las comunidades autónomas con que se produjeran precisamente en el ámbito de la hostelería y en ese sentido para salvaguardar a este sector hemos querido también eliminar todas las limitaciones que se establecen en el artículo correspondiente

que se aborden a través de un desarrollo reglamentario posterior de la ley que nos parece lo más adecuado en definitiva señorías ochenta y ocho

enmiendas que también muchas de ellas por su relevancia y porque además creemos que mejoraban el texto sustancialmente podían haberse tenido más en cuenta por los grupos que apoyan el gobierno

aplicación y de dudosa eficacia y

hay posibilidades también de mejorar los textos que se propongan y esperemos que esta vez los textos vengan de la mano del gobierno besterik gabe eskerrik asko

el valor de la ciencia y es que hoy es precisamente un buen día para hablar de este valor del valor de la ciencia porque gracias a la ciencia y a la investigación

al menos hacia la recuperación epidemiológica gaur baita bozkatu egingo dugu covid hemeretziaren aurrean

fidatu eta prest egon behar gara es verdad que las mascarillas parece ser que ya no van a ser necesarias en exteriores

es un alivio en sentido sobre todo

y es algo que nos hace ciertamente felices pero es que no podemos legislar según el día que nos sale hay que legislar

birusa bizirik dagoen bitartean ekar dezakeenaren aurrean debemos estar preparadas para futuros rebrotes y para posibles variantes por eso por eso creo que es muy valioso este acuerdo sobre esta ley

ezker anitza es un acuerdo sobre una ley que ya dijimos que sí que llega tarde pero aquí está y que ahora con este acuerdo

mejor hemos llegado nosotras a este parlamento con la intención con el objetivo de ser útiles para hacer una política constructiva

como la salud pública en los que siempre siempre estaremos dispuestas al diálogo y al acuerdo nos consideramos somos una izquierda

arreta lortzea eta abar siempre hemos considerado que el no por el no sirve de bien poco

hay que debatir y hay que ser constructivas y creemos que con la ley anti pandemia lo hemos sido y en futuros retos legislativos también pelearemos por mejorar las condiciones materiales de las personas sus derechos y su dignidad

nuestra seña de identidad así es como nosotras entendemos la política es decir saber cuándo hay que decir que sí y cuándo hay que decir que no no tenemos vértigo y no nos casamos con nadie creemos

saber decir que sí y saber decir que no de manera firme valiente y coherente en cada caso eso es lo que intentamos hacer

creo que hoy tenemos una buena ley y que en parte es también gracias a elkarrekin podemos izquierda unida

sustancialmente el marco sancionador siempre hemos creído más en la pedagogía que en el castigo y creemos que sí que había que regular de manera clara y segura cuáles son

a los derechos de la ciudadanía y también quiénes y cómo pueden tomar esas decisiones konstituzio kontrakotasuna gainditu

una ley mejor llevamos mucho tiempo

sin un sistema público de salud fuerte la población se encuentra indefensa ante situaciones como la sufrida esta ley no podía regular esto pero sí otras que vienen necesitamos buenas leyes y aquí

creemos que es necesaria no solo nos enfrentamos a retos legislativos en materia sanitaria además de esta legislatura emanarán las leyes medioambientales

la gestión de la política industrial la cuestión es van a ser herramientas que mejoren

nosotras tenemos la convicción de que deben serlo y nosotras vamos a pelear para aportar y para negociar como creo que sabemos hacerlo firmeza valentía

y altura de miras y como siempre lo que decía saber decir que sí y saber decir que no creo que

espera de nosotras eso es lo que a nuestro juicio significa ser una oposición responsable práctica y constructiva

que los procesos no siempre son rápidos ni fáciles trabajo y conseguir mejoras

presidenta egun on denoi el pasado veintiséis de marzo partido socialista y partido nacionalista vasco registramos la proposición de ley de medidas de gestión de la pandemia

eficaces en los supuestos de mantenimiento de un estado de alarma o una situación de emergencia sanitaria para responder a la situación de riesgo que vivimos por esta pandemia con medidas sanitarias y preventivas recogidas en el texto de la ley

de salud pública cuando presentamos la proposición de ley sabíamos que contábamos con una mayoría absoluta asegurada pero hicimos un llamamiento explícito y sincero al resto de las fuerzas de este parlamento para sumar

durante estos meses los tres partidos hemos tenido conversaciones hemos intercambiado documentos con el objetivo de lograr un acuerdo que finalmente conseguimos y con la incorporación de estas enmiendas el texto final de la ley que hoy aprobaremos sale enriquecido

que componemos esta cámara yo creo que es de justicia decir que si hemos logrado este acuerdo ha sido por el desarrollo de un ejercicio sincero

y que fue bien entendido por elkarrekin podemos izquierda unida al aceptar ese ofrecimiento y plantear su intención de abordar posibles mejoras al texto inicialmente presentado

y este es un hecho muy importante porque si de verdad se quieren explorar acuerdos unos y otros debemos ser conscientes de lo que eso nos exige a cada uno de nosotros

son muy claras primero como punto de partida

a que ese texto sea mejorado como así fue y segundo por parte del resto de grupos que quienes de verdad quieran explorar la vía del acuerdo planteen en sus enmiendas mejoras a ese texto mejoras no enmiendas a la totalidad encubiertas

y tres meses después de que iniciáramos el proceso el dictamen recoge las enmiendas que a nuestro juicio han sido presentadas con esa vocación de mejora del texto y del mismo modo deja fuera a aquellas que entendemos que han sido planteadas con otras intenciones en este sentido aunque reconoceré luego diferencias sustanciales en los planteamientos lo cierto es que las enmiendas planteadas tanto por vox como por eh bildu vienen a ser de facto una enmienda a la totalidad al proyecto que presentamos en el caso de vox sus enmiendas se resumen simplemente en negar la capacidad de autogobierno de euskadi en nuestras propias competencias en materia sanitaria

y que nosotros no podemos compartir eso de que nuestro país tiene una grave enfermedad que se llama estado de las autonomías pero viendo las enmiendas de vox parece que su único objetivo no era negar competencias al gobierno vasco porque lo cierto

debe ser que para vox el gobierno de españa también es otra enfermedad en resumen simplemente un sinsentido que lo único que pone de manifiesto son las fobias que semana sí y semana también se nos trasladan en esta tribuna en el caso de eh bildu sus enmiendas vienen a ser

son una enmienda a la totalidad porque de forma clara plantean una ley completamente diferente que excede y desborda el objeto de la proposición de ley que presentamos que como saben

impide cualquier aproximación a riesgo de dejarme muchas cosas en el tintero pero tenemos los minutos que tenemos

de gestión de pandemias en abstracto y en consecuencia sus enmiendas plantean cuestiones que en su caso serían propias de una ley de salud pública pero no de esta que hoy tratamos nosotros ya lo dijimos desde el principio nuestra intención no ha sido la de hacer una ley general que sea aplicable a cualquier situación epidémica que se pueda presentar en un futuro pero por un simple principio de realidad porque las particularidades de cada epidemia la forma de transmisión la virulencia o el grado de mortalidad hacen que sea muy inocente

puedan servir también para responder a otro tipo de crisis sanitarias por eso esta es una ley concreta para una situación concreta la gestión de la pandemia de la covid

se recoge el compromiso de abordar en esta legislatura un nuevo plan y una nueva ley de salud pública

para incorporar una nueva estrategia de salud pública acorde a aquellas nuevas amenazas a la salud desarrollando la idea de sanidad comunitaria y apostando por la tecnología y la investigación

para la prevención protección y detección de riesgos para la salud comunitaria

dicho esto yo sí quiero aprovechar para rebatir algunas ideas que se han lanzado y que no puedo dejar pasar tal y como ya les dije en la ponencia y en la propia comisión

de quienes hemos propuesto esta ley saltarnos la tutela judicial y mucho menos cuando pueden estar en juego derechos fundamentales pero es que además eso sería

porque vivimos en un estado de derecho y esa tutela judicial siempre va a existir y el ejemplo más claro lo hemos vivido aquí en euskadi donde incluso con un estado de alarma vigente

sin estado de alarma siempre va a estar ahí también como no puede ser de otra manera faltaría más pero como hemos visto que se insistía en esto no hemos tenido ningún problema

que de forma más contundente limita expresamente la vigencia de medidas que sean restrictivas de derechos fundamentales solo mientras esté vigente una declaración

y respecto a lo que nos han comentado de que se haya hecho mediante una proposición de ley que haya tenido tramitación urgente y otras dudas competenciales que se han planteado yo me remito a lo que ya

como saben el señor feijóo en galicia planteó su ley antipandemia a través de una reforma legal

proposición de ley con tramitación urgente y en esa ley su compañero de partido el señor feijóo ha tratado de explorar las competencias propias de galicia y en esa exploración resulta que ahora está negociando en una comisión bilateral un acuerdo extraprocesal

yo me conformo simplemente con que ustedes nos permitan explorar nuestras competencias nuestro autogobierno de la misma manera que lo ha hecho el pp en galicia

en cualquier caso lo repito expresamente le agradezco de forma sincera señora garrido la actitud que ha tenido en la ponencia y en la comisión

diré algo que también me parece bastante importante que ya dijimos cuando presentamos la proposición de ley creo que esta puede ser la primera vez en la historia en la que

tiempo posible vigente o incluso nos encantaría que no fuera necesario que llegue a estarlo jamás porque eso significaría que ya no hay una situación

pero nosotros tenemos la obligación de plantear un instrumento efectivo para ese mientras tanto conseguimos el objetivo de volver a la normalidad que es simplemente el escenario más seguro también jurídicamente hablando así como por si existiera una reversión de la situación que por supuesto nadie desea

con una seguridad vacunar vacunar y vacunar que es el camino más rápido y seguro

al mundo que conocíamos nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

implican una modificación de gran intensidad de la proposición de ley el espíritu de las enmiendas comenzando por la propuesta de modificación del título de la iniciativa

ojalá no se aplicara nunca y eso ya en sí mismo significaba cuando lo dijimos y significa ahora que nuestra propuesta

la del covid diecinueve en exclusiva y que su vigencia solo duraría lo que tardara en desaparecer

y que nos mata y cuanto menos dure la pandemia menos durará la ley

hemen gauza bat erabakitzen zen eta inguruko erkidegoetan kontrakoa eso sí esa seguridad jurídica se basaría según lo que dijimos en exprimir al máximo nuestras competencias sin con ello romper el marco jurídico actual y aceptando las normas básicas reguladoras incluso aunque a veces muchas veces

oportunas ni gestionadas con el necesario común acuerdo por último propusimos una ley abierta a todas las aportaciones que quisieran construir una ley con nosotros y que aceptaran los principios en los que basábamos la susodicha proposición salvo elkarrekin podemos

ningún otro grupo lo hizo por ello tuvimos que analizarlas en el escaso espacio de tiempo que tuvimos entre la recepción de las enmiendas y la reunión de la ponencia

y otros eran quienes no aceptando el marco propuesto sugerían leyes totalmente diferentes empezando por estos últimos el grupo mixto con quienes poco me voy a parar simplemente sugerían vía enmienda una ley que rompe el marco competencial actual

y en todas y cada una de sus enmiendas reflejan un sometimiento a la unidad nacional en las decisiones a la uniformidad y a la renuncia de nuestras competencias

proposatzea baizik lo grueso de sus enmiendas tiene que ver con una nueva ley que contemplaría todas las posibles pandemias que se pudieran producir en euskadi y eso no es la intención de nuestra proposición que como ya les he dicho desde el principio solo pretendía abordar

les puede parecer poco ambiciosa puede que sí pero es la que ahora necesitamos

para posteriores pandemias estará ya les hemos dicho la ley de salud pública prevista en el calendario legislativo y a la que deberían aportar o estas enmiendas o todas las que ustedes deseen

no son adecuados para la implantación del modelo de cogobernanza pues claro que no pero no pueden ustedes obviar la realidad jurídica y organizativa del estado porque no les guste a nosotros tampoco pero sabemos que hacer como que no existe pues eso no aporta nada también los

con el intercambio de información entre los dos pero ustedes los aceptan y los defienden a tope en sus enmiendas que me parece muy bien pero solo desde la negociación el intercambio y la complicidad se pueda avanzar

mucho decir por cierto que esta ley debería ser un decreto y ustedes ni más ni menos crean un puesto de director de enfermedades infecciosas por ley

esa persona que dicen tiene que ser independiente será elegida

aplicándole previamente el independenciómetro el medidor de independencia tomará las decisiones sobre y vuelvo a leer textual cierres perimetrales

casi nada añaden como función del gobierno y vuelvo a citar textual

para que las decisiones se ejecuten en el menor plazo posible no se lo pasa al consejo de gobierno para que lo debata no para que lo apruebe y lo publique

porque no le dejan derecho a corregir lo que le proponga el epidemiólogo independiente eso sí

independiente se equivoca no habrá que cesar la reprobación será para el lehendakari que sancionó

en definitiva sus enmiendas rezuman una hipertecnificación del gobierno vasco técnicos debe haber y los hay pero de ahí a que toda decisión sobre la gestión de la pandemia la tomen epidemiólogos de reconocido prestigio a los que por cierto no se sabe

que por supuesto y usted lo sabe señora ubera los hay independientemente de que no sean los que usted quisiera se trata y esta proposición de ley lo deja claro de que los técnicos asesoren al gobierno el cual en última instancia decidirá sobre las medidas a tomar

sino en múltiples variables de otro tipo como los de carácter social económico que por cierto los epidemiólogos al menos desde su perspectiva científica no saben valorar

con esas propuestas no podemos estar de acuerdo y por eso no aceptamos sus enmiendas por proponer una ley distinta además de que la nueva ley es inaceptable desde nuestro punto de vista político y democrático por esa regla de tres por ejemplo qué hacemos usted señora ubera y yo debatiendo como posesos desde octubre sobre vacunas medidas preventivas rastreos y yo qué sé que vengan dos epidemiólogos independientes uno de su independencia y otro de la mía que debatan entre ellos eso sí a final de mes el sueldo para usted y para mí por si acaso

que lo hemos hecho no ha habido manera de encontrar una sola enmienda aprobable y es que insisto han presentado

luego están las enmiendas presentadas por podemos y pp grupos que han entendido nuestra proposición y que han propuesto mejorar con sus enmiendas es cierto que con podemos

lo que ha llevado a que aceptemos una mayoría de las mismas que he de reconocer la mejoran

en garantizar derechos laborales o derechos de reunión así como en mejorar bastantes aspectos punitivos de la ley y vuelvo a agradecer el trabajo que se ha hecho

algunas las hemos aceptado y otras no de las que tienen otro contenido

epidemiológica o que se pida una reserva estratégica todo eso existe ya lo conocen

para esta epidemia y si van a seguir mientras dure la epidemia para qué pedirlas

propuestas en los diferentes niveles medidas que hasta ahora se han venido aplicando y que en términos generales han venido funcionando y que entendemos

en tanto han propuesto en positivo sobre nuestra previa propuesta alejándose de sugerir

y esta es en definitiva nuestra posición sobre las diferentes enmiendas presentadas a nuestra proposición de ley que han derivado en un informe de ponencia en el que estamos de acuerdo anunciando

que las enmiendas no incorporadas al texto y que los grupos mantienen no las vamos a apoyar sosteniendo la posición defendida en la ponencia y entendiendo

respecto a las perspectivas que nos habíamos planteado al presentar esta proposición y que cualquier otra enmienda no aportaría ninguna mejora y sí probablemente

gracias señora presidenta señor rico veo que no renueva sus argumentos que insiste

sí por supuesto con orgullo defendemos la centralización de competencias sanitarias más aún después de los despropósitos de los últimos dieciséis meses del que han sido arte y parte ustedes los socialistas

aquí el pnv y no no se equivoquen no intentamos quitar competencias al gobierno central sino todo lo contrario queremos que los niveles de alarma

los mismos que aconseja la oms y los mismos que respeta el ejecutivo español por supuesto por qué estamos aquí hoy debatiendo esta ley

la mentira al ejercicio de sus responsabilidades algo que a nadie en esta cámara sorprende anunció una reforma de la ley de salud pública

para después dejar su promesa en el cajón de incumplimientos a estas alturas debe tener ya

y por supuesto señor tellería nuestras enmiendas hubiéramos querido no tener que hacerlas porque hubiera sido una enmienda a la totalidad en caso de haber tenido la posibilidad de hacerlo muchas gracias

claras al señor rico simplemente señalarle se lo dije en comisión

es la que es no me la he inventado yo y no la he entendido mal

ese inciso esa frase porque creemos que obviamente todas las medidas están sujetas a ratificación judicial y sobretodo

y al control judicial como no podía ser de otra forma por eso nos extrañó esa referencia y la hemos

para un posible recurso ante las medidas que se puedan adoptar por esta ley ante la jurisdicción contencioso administrativa y los tribunales correspondientes

a ver si al final el que va a recurrir la ley que sale aprobada no es vox y va a ser el gobierno de españa o el partido socialista a nivel nacional pero

en galicia señor rico se ha modificado que no tiene nada que ver una ley ya en vigor la ley de salud

corriendo sin las garantías suficientes al traer este texto a través de los grupos que apoyan al gobierno y no un proyecto de ley

blindado que ustedes han alcanzado con elkarrekin podemos

obviamente ningún inconveniente en que se ensanchen los acuerdos pero aquí los acuerdos se han ensanchado

que más allá de las enmiendas que todas las hemos analizado y yo misma me he sorprendido porque son unas enmiendas que no tienen mucho contenido se ha tratado de vestir un acuerdo porque tocaba

que las han tenido y las quieren tener aquí yo en ese sentido creo que hubiera sido más

de la ley pues haber hecho un esfuerzo por parte más allá de que nos hayan aceptado y yo se lo vuelvo a agradecer esas quince enmiendas pero

pues adolecía de muchos defectos formales y con redacciones no correctas que más allá

yo creo que hubiera sido deseable por tener la oportunidad de mejorar el contenido de esta ley pues haber prestado más atención yo creo a algunas de las enmiendas

interesantes digo por eso de ensanchar los acuerdos pero aquí parece ser que los acuerdos aunque no sean de mucho contenido se ensanchan con elkarrekin podemos bueno pues es una elección y ustedes sabrán lo que

a los apoyos que tiene la mayoría de este gobierno cómo los quieren en ese sentido ampliar

hecha deprisa y corriendo cuya tramitación ha sido absolutamente

acelerada recordar que luego se subsanó pero se quería hacer sin una ponencia incluso enmendar esa decisión y que por lo menos se hiciera una sesión de la ponencia y de dicha ponencia

un informe no ha habido posibilidad de tener por lo menos con nuestro grupo un debate sosegado y en profundidad sobre una ley de dudosa aplicación por su propio contenido y por escaso recorrido como

nos ha dicho que la situación de emergencia sanitaria puede decaer y que esta ley está circunscrita a un escenario de emergencia sanitaria por lo tanto la viabilidad el recorrido de una ley

circunscribirse sus propias medidas y previsiones pues obviamente el recorrido como todos nos podemos imaginar

posturas y nuestra posición en la primera intervención yo sí quiero

el importante consenso con el que nace esta ley que va a contar con el voto a favor de cuarenta y siete de los setenta y cinco parlamentarios y parlamentarias que hoy nos sentamos aquí un consenso conseguido en base al debate sincero y la disponibilidad de partido socialista partido nacionalista vasco y elkarrekin podemos izquierda

preventivas y sanitarias y para responder como he dicho antes a las situaciones de riesgo a las que tendremos que

importante destacarlo porque algunos grupos han querido centrar parte del debate en la anécdota o planteando la pregunta de si esta ley sería realmente necesaria habida cuenta de que en estos momentos

con un escenario que va evolucionando favorablemente y en el que no se puede descartar que desaparezca la situación de emergencia sanitaria y a mí me llama la atención varias cosas con respecto a la anécdota que si la ley recoge la obligatoriedad de la mascarilla y resulta que se va a dejar de ser obligatoria en exteriores pues sí pero alguien se ha leído esta ley

se recoge la posibilidad de que la autoridad sanitaria pueda eximir de su uso añadiendo nuevas excepciones

cuando se hace esta aseveración que se ha hecho y con respecto a si esta ley es necesaria a la vista de los buenos datos que estamos teniendo a mí me llama

y curiosamente quienes están haciendo este planteamiento ahora

durante toda esta legislatura durante todos estos meses en qué quedamos

la segunda es que si algo hemos aprendido de esta pandemia aunque parece que no todos lo han aprendido demasiado bien es la volatilidad de los escenarios y la necesidad de prudencia

y se lo he dicho en la primera intervención está muy bien subir aquí a decir cosas pero nosotros al menos nosotros tenemos la obligación de plantear un instrumento

conseguimos el objetivo volver a la normalidad y para ese por si acaso se vuelven a escenarios

y además me resulta curioso que ese planteamiento venga por parte de pp y eh bildu porque de vox yo lo daba

desde el treinta y seis pero decía que me llamaba la atención que

en el caso del partido popular señora garrido a quien vuelvo a aprovechar para agradecer

debate si esta ley nace muerta

entonces serán el mismo grado entiendo entiendo yo por eso le he dicho que yo me conformo simplemente con que ustedes nos permitan explorar

no pido más pero tampoco menos y con respecto a la señora

hemos estado oyendo aquí que nos tenemos que adelantar a la pandemia que no podemos confiarnos pero parece que hoy nos dice todo lo contrario al decir que esta ley nace muerta por los buenos datos que se están teniendo entonces qué tenemos que hacer cruzar los dedos para que

esa tiene que ser la respuesta de este parlamento cruzar los dedos para que no empeoren los datos

hoy a la pandemia y dejar preparado un escenario por si sigue siendo necesario o en algún momento vuelve a ser necesario y yo lo digo claramente hoy una gran mayoría de cuarenta y siete parlamentarios y parlamentarias vamos a votar a favor de esta ley por responsabilidad y esa responsabilidad para comenzar a explorar un escenario jurídico no se riñe

que mejora la situación y para acabar yo quiero poner en valor el ejercicio de diálogo y consenso que se ha realizado con las mejoras del texto incluido el texto que hoy aprobamos es un intento de explorar nuestro autogobierno para dotarnos de

y junto a esto nosotros los socialistas seguiremos empeñados en seguir desarrollando el mejor instrumento con el que contamos que es la vacunación porque hoy aprobamos una ley aquí por responsabilidad sí

ninguna vacunar vacunar y vacunar tenemos que seguir todos adelante fomentando este éxito colectivo que es el proceso de vacunación

los artículos de esta ley que comprenden medidas de contención de la pandemia de covid diecinueve estarán en vigor mientras se encuentre vigente la declaración de emergencia sanitaria contenida en el artículo

que si la ley nace muerta que si las mascarillas parece que la mascarilla es la clave esencial de esta ley

socialmente se haya convertido en el símbolo de una pandemia

media cara pero no es importante y en cualquier caso ya veremos qué mascarilla queda al final

ahora eso no quita que a nosotros nos siga pareciendo mal

desde el gobierno central de poner una ley sin contabilizar o igualando a todos cuando nosotros estamos en ciento once galicia en cuarenta andalucía ya está en ciento ochenta no estamos todos igualados y cada uno debe

siga ahí la mascarilla por eso en cualquier caso vuelvo a insistir ojalá no se aplicara esta ley estaríamos todos mucho mejor tendríamos una ley guardada habría sido un ejercicio de haber hecho una ley de pactar con unos y otros si no la aplicábamos por qué

eso sería fenomenal sería la mejor noticia que yo tendría el resto

es que sus enmiendas vuelvo a insistirle son otra ley

en enmiendas parciales que usted le gusta llamarle propuestas

son ocurrencias ocurrencias que es distinto mire el real diccionario de la academia son ocurrencias además del momento porque alguien ha leído una información en un periódico de lo que ha hecho otro país otra región una aldea que parece que le ha ido bien nos ha traído aquí

hemos hecho turismo pandémico en ese sentido hemos hecho turismo pandémico pero no se ha fijado en euskadi en nuestra realidad social en nuestra sociología en nuestra economía en cómo somos de verdad

aquí y cómo nos comportamos aquí y cómo hacemos normas para adaptarlas a cómo somos aquí hace un año ante la convocatoria de elecciones

usted y sus compañeros gritaban por ahí

a los que estaban en las mesas electorales hoy el día dieciséis de este mes cuando la incidencia era de ciento treinta y ocho por cien mil usted pedía en comisión

vale si en diciembre transacciona con nosotros

para que se informe de los positivos desde un sistema centralizado y coordinado en abril nos viene con que se regalen a cada ciudadano dos test a la semana y que ellos mismos ya si eso dan positivo se autoproclamen positivos en una app ad hoc

la vacuna que quieran y que en todos los casos firmen un consentimiento informado que pide que les pongan astrazeneca y que no firmen nada mire es el modelo

arrimen ascuan sardinen propian que es

algo que le parezca curioso y oportuno para luego sobre todo contrario a lo que hace el gobierno también para luego proponerlo como si fuera una generosa aportación a la mejora de la gestión de la pandemia cuando en realidad es

para envenenar el ambiente si el gobierno hace a usted propone

imagínese que el lehendakari dentro de dos semanas como usted dice que ha dicho va a quitar la emergencia sanitaria usted va a salir diciendo que no está bien

estoy seguro mire en el fondo tanto ir a madrid

han aprendido lo peor que por allí funciona la oposición destructiva e inmisericorde con el gobierno criticando haga lo que haga y han decidido liderar ese estilo opositor aquí en euskadi con quienes

muy aprendida ya mírese no tiene más que mirarse y verse hoy en las votaciones

y así llevamos toda la pandemia haciendo mientras ustedes intentan no dejar hacer a pesar de lo cual

eztabaidatu nahi ditugu la ley catorce barra dos mil siete nació

político del consenso social impulsado también por la labor de aquel gobierno y de mi formación política en particular y es una ley que nadie

de esa ley sino que hay un consenso sobre la importancia del desarrollo de mantener y si acaso ampliar algunos de los aspectos de esa legislación

como actor fundamental de la cooperación internacional es decir el papel fundamental de la sociedad

como de la sociedad civil organizada de los países del sur en el desarrollo de las políticas de cooperación internacional horrexegatik esaten dugu

la importancia de las ongd y de la cooperación descentralizada es un tema que está fundamentado

como actores principales y la sociedad civil como actor principal en un modelo que

definiendo como un modelo de colaboración público social y público comunitaria que nosotros apostamos por profundizarlo en la teoría

en lo que está ahora mismo en vigor en la ley es una ley muy avanzada y que tiene un compromiso presupuestario muy claro en su disposición segunda y hoy

tantos años después que ese compromiso está incumplido por el gobierno vasco y por tanto es una de las reivindicaciones principales que tiene que estar

del nuevo texto el cumplimiento presupuestario de la disposición de la ley

es decir el cero coma siete por ciento del presupuesto ezinbestekoa iruditzen zaigu baita ere koherentzia politiken garrantzia eta koherentzia politiken garapena

que muchas veces el desarrollo lo que había desarrollado era la desigualdad precisamente para eso es fundamental desarrollar la coherencia de políticas no solo en la cooperación internacional sino el conjunto de la acción del gobierno gainera iruditzen zaigu funtsezkoa ezinbestekoa

necesitamos que de este proceso salga una política pública de cooperación al desarrollo fuerte que no esté sujeta a vaivenes políticos y con fuertes compromisos

eta hori txertatzen da erdibideko honetan un reconocimiento del papel central de las ongd en el desarrollo del modelo de cooperación internacional y descentralizada que hacemos

euskadi y un compromiso irrenunciable al cero coma siete por ciento y además como no podía ser de otra manera en un proceso de nueva ley

actuales que tenemos en el modelo de desarrollo que los citaba antes y el cuarto lankidetza politikaren helburua garapenaren eredua aldatzea izan behar da

un punto que se introduce que es una reivindicación

que es la de agilizar los procesos burocráticos que tienen que sufrir y padecer o sufrir o padecer

para desarrollar los proyectos y esto no solo es una cuestión de preferencia de gestión de los proyectos sino que también es un tema que tiene una especial relevancia en cuanto a la eficacia de la ayuda

gracias presidenta consejera señorías buenos días yo voy a ser muy breve porque quiero anunciar que yo me sumo al acuerdo creo que la enmienda de totalidad que nosotros presentamos

de transacción nosotros hablábamos como elemento general porque yo creo que cuando hablamos y vemos las recomendaciones lo que nos dice la coordinadora de ong de euskadi

con las cosas que hay que hacer yo creo que esas recomendaciones pueden marcar también una pauta

el acuerdo de las nuevas líneas de las nuevas claves de los nuevos elementos

interesantes así que yo veo reflejada desde luego mi enmienda

dentro del acuerdo alcanzado y de la transacción mi grupo siempre ha trabajado en esta cámara por fortalecer las claves de la cooperación al desarrollo que se realiza desde las estructuras del gobierno siempre lo ha hecho y lo hemos hecho decididamente y además con eficacia y con reconocimiento de que

en negociaciones presupuestarias ahí están o también lo hemos hecho en las propuestas de resolución de las orientaciones generales de planificación estratégica debatidas en diciembre de dos mil diecisiete son orientaciones generales

plurianual dos mil dieciocho dos mil veintiuno de cooperación al desarrollo que luego

de lo que presenta también esta enmienda de transacción en relación con la filosofía de la cooperación al desarrollo pero también hacía propuestas muy concretas en relación

y el incremento económico para ese plan ese programa plurianual hasta dos mil veintiuno o sea que en ese sentido tenemos que decir que la experiencia y nuestro trabajo ha estado ahí y por eso nos sentimos bien legitimados para exigir un esfuerzo también al gobierno un esfuerzo

deber de reforzar esa cooperación una cooperación como seña de identidad una seña de identidad histórica en el país vasco una seña de identidad histórica

o ámbitos públicos o el propio gobierno antes la lideraban

la lideraba la iglesia pero siempre ha sido ejemplar

ha hecho dar determinados pasos atrás en algunos esfuerzos públicos pero bueno en cualquier caso yo creo que ese mantenimiento o esa seña de identidad que es nuestra pues yo creo que

conformación de una ley tiene que estar ahí y se tiene que notar es decir también bueno otros instrumentos normativos han sido también bien recogidos asumidos han servido de referencia a otras normativas de otras comunidades autónomas o de otros sitios o sea que en ese sentido pues yo creo que ese esfuerzo tiene que estar ahí por eso

incide en que nos preocupamos antes de la elaboración de la ley porque esa ley se haga bien y queremos participar

hoy es época y tiempo de cooperación y de colaboración y de hacerlo además entre

muchos más gobiernos muchas más estructuras receptoras de fondos de cooperación muchas más organizaciones internacionales de mucho ámbito

en ese sentido hay una estructura mucho más amplia por eso hay que ser más finos hay que ser más inteligentes hay que perfeccionarse en este tema también porque hay muchas más posibilidades y aprovechamiento de estructuras que están ahí para que la cooperación sea mucho más eficaz hoy las nuevas claves en la cooperación pues están ahí no

lo fundamental pero eso en todas las políticas públicas pues los objetivos como ya se ha dicho la agenda dos mil treinta

lo más básico de todo que son los derechos humanos los marcos de colaboración en muchos ámbitos

para conseguir esa mayor eficacia por eso una modernización de la actual normativa es conveniente y es conveniente hacerlo teniendo en cuenta el trabajo que sobre el que ya actúan

organizaciones no gubernamentales que muchas hemos tenido la oportunidad durante todos estos años en el parlamento vasco por el buen trabajo también que hemos podido realizar en equipo en algunas materias

el trabajo de organizaciones no gubernamentales o tantas personas que forman parte de esas estructuras y que han entendido cómo mejorar además por eso mismo lo que nosotros nos referíamos de esas recomendaciones esas estructuras esas personas que han trabajado a pie de obra de una manera muy eficaz

de actuación gubernamental procedimientos o procesos administrativos o burocráticos muchas veces pues ya sabemos cómo son modelos de cooperación

elementos fundamentales nosotros entendemos que la enmienda de transacción recoge el elemento básico una previa a lo que tiene que ser el proceso de elaboración

la enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias presidenta buenos días consejera consejera señorías egun on guztioi buenos días a todos bien yo creo que lo que corresponde

una extensa y sólida trayectoria en materia de cooperación al desarrollo y que por ese motivo la cooperación vasca es reconocida internacionalmente

ante la propuesta de cambio de la ley vasca de cooperación y según lo manifiesta lo atestiguan las abundantes evaluaciones externas

éxitos con indicadores objetivamente verificables con base en este documento señorías el grupo parlamentario elkarrekin podemos el señor martínez

esta moción relativa a la política de cooperación al desarrollo derivada de la interpelación que se substanció efectivamente en el pleno de control de hace

en dicha interpelación efectivamente y en un primer momento el señor martínez incidía en la idea central de la inexistencia de ni de urgencia ni de necesidad en orden a proceder

de la ley de cooperación del dos mil siete alegando que la ley actualmente en vigor pues era fruto de un gran consenso político y que en realidad no se habían producido circunstancias objetivas de entidad suficiente que motivaran su modificación pero lo cierto es que al final bueno al final de su intervención venía

expreso o por lo menos digamos que más convencido

pues bueno de necesidad de actualizarla eso sí señalaba expresamente con el objetivo de fortalecer las políticas de cooperación y sobre todo con el consenso de tanto políticos como social que suscitó la ley anterior y sobre todo con base

la coherencia de políticas públicas y también la alineación con la agenda

del curso de la interpelación como el como transcurrió con la respuesta de la consejera pues permitían afirmar y permitían

que y también permiten desde luego afirmar que es mucho más muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa y que con esos mimbres pues era de esperar en una moción que permitiera el acuerdo mayoritario de todos los grupos parlamentarios como así ha sido y en ese sentido pues creo que toca efectivamente felicitar y agradecer a todos los grupos su disposición voluntad y su capacidad para el acuerdo porque hemos conseguido acordar no solamente un alcanzar un amplio acuerdo sino que además se suma en este caso

que todo este parlamento se posiciona de manera

lo que sí creemos señorías nosotros desde el grupo

desde que se aprobó la ley del dos mil siete y el mundo en el que vivimos ha cambiado mucho ha cambiado

es conveniente que vayamos adaptando nuestro paso acompasado al ritmo de los cambios

y obviamente nos está interpelando a todos a encontrar para encontrar implementar medidas transformadoras en busca de un desarrollo

necesitamos también un sistema de cooperación ambicioso que responda a los retos globales y que promueva la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible una cooperación que sea feminista ecologista que con con la ciudadanía que refuerce su presencia en ámbitos locales con otros en otros lugares del planeta

de manera eficaz también a las emergencias humanitarias lo dicen todos digamos los actores y yo creo que todos yo creo que

compartimos esta visión y coincidimos en definitiva en la necesidad de generar un nuevo marco normativo que nos permita enfrentarnos mejor y con más herramientas a esas realidades y desafíos que

sino también en el presente que nos está tocando vivir y yo creo

con seguridad pues bueno que el gobierno nos remita un proyecto de ley en línea con esos compromisos con esos enfoques

del trabajo descentralizado de la educación para la ciudadanía global para en definitiva tener una cooperación transformadora que contribuya

así lo esperamos y no solo porque así lo afirmó y lo confirmó la consejera artolazabal en su intervención

de los grupos que apoyamos al gobierno y que se recoge taxativamente en el acuerdo de gobierno para esta legislatura

y esos acuerdos lo que hacen es precisamente manifestar claramente que nos alienamos a lie na mos alineamos alienados

con la agenda dos mil treinta de los objetivos de desarrollo sostenible y constatamos que la política

entendida únicamente como un ámbito de acción especializado sino como una parte muy importante como una estrategia global de desarrollo desde un enfoque repetimos siempre

para el desarrollo efectivamente toda la política de cooperación ha de aplicarse a toda la acción del gobierno vasco y se hace por lo tanto imprescindible

legal que corresponda y responda al escenario actual y a la forma en la que la propia administración vasca debe impulsar políticas de desarrollo para articular una cooperación descentralizada se establecen una serie de compromisos si ustedes han tenido la ocasión de leer el acuerdo de gobierno

entre otras cosas porque hay alguno que expresamente blinda garantiza un compromiso presupuestario también lo dijo la señora artolazabal en su intervención y blinda el siete sabemos lo que ha ocurrido con el

también esto está blindado y así lo hemos recogido en esta enmienda y

e impulsa el compromiso y las alianzas entre nuevos agentes de desarrollo al que hacía mención el señor

ya ha hablado de la coherencia de políticas ya ha hablado del compromiso con la educación para la transformación social cuyo eje central desde luego también insiste en el acompañamiento a la ciudadanía para promover el pensamiento crítico y el compromiso social e individual y el compromiso con la calidad el impacto y la evaluación

de todas las políticas en ese sentido así que todas estas cuestiones más allá de algunas apreciaciones personales error

aparte de algunas apreciaciones personales yo creo que son cuestiones que nos apelan a todos directamente que todos hemos asumido

como propias y que se recogen perfectamente en la enmienda transaccional

pues eso un consenso unánime logrado en esta iniciativa y este consenso señorías tiene algo muy importante y tiene un valor muy importante en sí mismo porque en definitiva

sentido no nos permiten demostrar que hay veces que en este parlamento hacemos política de cooperación para el desarrollo de acuerdos y consensos importantes

es que sería interesante que fuese mucho más a menudo pero

argi dago mozio prebentiboa dela decía usted en su intervención a la consejera

y ha repetido hoy que desde su punto de vista no es ni urgente ni necesaria la reforma de la ley y es legítimo que ustedes piensen eso pero le recuerdo que el partido nacionalista vasco se presentó a las elecciones con un programa electoral que incluía la reforma de esta ley y le recuerdo que cada uno recibe la confianza que recibimos y le aseguro que en nuestro programa nos compromete ante la ciudadanía

y que cuenta con su confianza mayoritaria lo mismo que le compromete el calendario legislativo que fija para el segundo semestre de dos mil veintiuno la aprobación del proyecto de ley por tanto el proyecto de ley se va a presentar vamos a cumplir la palabra dada y vamos a responder a la confianza recibida y llegará

el momento procesal del debate en profundidad sobre la ley debatiremos sobre sus objetivos instrumentos y sus políticas y lo haremos con una voluntad constructiva con el objetivo de reforzar los aspectos centrales y positivos de nuestra cooperación con el objetivo también de identificar las áreas de mejora observadas en estos veinte años de experiencia de cooperación vasca que existir

con el objetivo de seguir aplicando la evaluación y mejora continua

las razones que hacen necesaria de la ley y que nosotros compartimos destaco siete razones

la ley uno barra dos mil siete de cooperación no se adecua a los retos globales del momento actual y cuenta con enfoques limitados en cuanto a la coherencia de las políticas para el desarrollo dos el escenario internacional ha cambiado usted mismo lo reconocía en la interpelación

se requiere financiación sí pero se requiere algo más intercambio de experiencias

tres la actual ley promueve un modelo de demanda lo que

y limita la posibilidad de establecer una política pública de cooperación que la señora etxebarrieta demandaba y que yo comparto plenamente cuatro

cinco la ley recoge una discutible y confusa distinción entre tipologías modalidades e instrumentos de cooperación seis

que de una ley y siete la ley da escasa relevancia a temas de importancia como la rendición de cuentas la transparencia la evaluación

solo estas son razones ya para actualizar avanzar y mejorar y es indudable sí y no cuestionamos

de cooperación descentralizada pero para mantener ese carácter referencial y para seguir mejorando debemos acometer y es en lo que estamos

conozco sus temores no los comparto pero ahí están es que no son nuevos han acompañado a la cooperación vasca desde sus inicios son en parte los temores de quienes han construido nuestro modelo de cooperación el temor

lugar a temer nada este proyecto de ley no nace contra nadie su misión es mejorar un modelo que consideramos valioso y su objetivo es trabajar

y por eso precisamente ha sido tan fácil llegar a una transacción hoy

y por alguna cosa más porque compartimos los objetivos principales en relación con la construcción de un mundo mejor

y lo voy a decir en estos días en los que mostrar los sentimientos en público le puede acarrear a uno el calificativo de nenaza por razones personales

hemos dedicado ya unas cuantas horitas fuera de foco a trabajar estos temas a compartir estas reflexiones

a compartir esos deseos esas utopías en ocasiones y porque eso y alguna hora también de vallenato de cumbia en la ballena azul que

ayuda mucho a la elaboración de estos consensos y por eso quiero mostrar ese sentimiento aun a riesgo de que se me llame nenaza para decirles

muy gratificante todas esas horas que he compartido con ustedes que me han hecho creo ser mejor persona mejor parlamentario y poder presentar hoy con satisfacción este acuerdo

decía que no hay lugar para temer nada yo espero y deseo que este acuerdo sea el preámbulo de que podamos construir

esto es los cinco objetivos que perseguimos y queremos compartir con la reforma uno abordar los nuevos desafíos globales crisis climática profundización de la desigualdad

falta de justicia de género o transición digital entre otros dos

desinteresada y en una sociedad organizada y activa tres consolidar una nueva arquitectura institucional que mejore la coherencia y corresponsabilidad entre los agentes vascos a favor del desarrollo humano sostenible inclusivo cuatro ampliar la base de movilización de los recursos solidarios de euskadi

cinco avanzar hacia el modelo de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible desplegar la nueva ley desde las propias administraciones y también en su interior

sustanciamos una interpelación en relación a la vacunación de los

de doce años no institucionalizados

discapacidades muy severas niños que tienen problemas conductuales

niños que no pueden hacer prácticamente nada por sí mismos niños que no pueden portar mascarilla niños que son un vector de contagio

las comisiones correspondientes porque nos parecía que era un grupo muy vulnerable susceptible de atender

vacunaciones en relación a las estrategias que establecían y establecen las recomendaciones para la vacunación de los diferentes

en planificar un proceso de vacunación y por eso también muchas veces

específico de vacunación para saber dentro de cada grupo qué colectivos se podían

esas recomendaciones de la estrategia nacional y digo esto porque ya claramente en la séptima estrategia del once de mayo se posibilita

a los mayores de doce años que estén en estas situaciones y por ello nosotros entendimos sobre todo a partir de esa fecha porque sí que es cierto que antes ha habido algún criterio cambiante pero desde luego a partir

sí había ya una habilitación para que se pudiera vacunar

siempre que la agencia

las vacunas correspondientes que así se hizo el veintiocho de mayo nosotros hemos tenido conocimiento hemos tenido oportunidad de seguir este caso

que conocemos y se está produciendo una vacunación del colectivo de estos niños en una situación tan vulnerable de forma absolutamente excepcional sin un criterio general que no entendíamos

de ya vacunar a estos niños en esta situación niños repito grandes dependientes mayores de doce años no institucionalizados pues no se les vacunará no solo a ellos sino a sus cuidadores mayoritariamente son sus padres y se estuviera haciendo con un criterio absolutamente

a base de la presión que se estaba ejerciendo

a vacunar bueno obviamente a mí se me comunica por parte

nacionalista vasco que esta situación se estaba subsanando a raíz de

y bueno entendemos que está siendo así yo no tengo noticias salvo que los portavoces de los grupos que apoyan al gobierno me digan lo contrario que ya se haya vacunado

las personas cuidadoras que como digo preferentemente son sus padres pero sé que se está en ello

agradecer que ya por fin yo le decía a la consejera que mirara a los ojos a los niños y a las familias de estos niños en el pleno de hace dos semanas

que había que atender era de justicia y son situaciones además muy muy delicadas y suponen un grave impacto emocional para las familias como digo está siendo así no sé si están todas las vacunaciones finalizadas pero

y las llamadas constantes a que se atendiera la situación de estos niños y estas familias han sido constantes al final parece que han tenido su eco y en ese sentido

sí que es cierto señora consejera que esperemos que la finalización de la vacuna de estos niños en esta situación y las familias se culmine lo antes posible y ya le digo

retiramos nuestra iniciativa eskerrik asko garrido andrea

desde el escaño bien al señor iriarte

realmente no sé de qué moción estaba hablando no lo sé porque no ha hablado de nada de lo que era el punto que además ha sido

una vez abierto el debate y nos encontramos

es lo mejor simplemente decir que con respecto a esta cuestión hay que tener claro cuál fue la sucesión de los hechos el viernes once de junio se hace una interpelación

en la que la consejera contesta y deja claramente diferenciado qué es lo que sucede con los mayores de dieciséis años que se encuentran en esa situación y con los menores de esos dieciséis años y dice se puede leer en el diario de sesiones que en el momento en que la comisión de salud pública determine que pueden ser vacunados

esa misma semana creo recordar que fue el martes la comisión de salud pública toma la decisión de integrar

el departamento de salud dice que se pone a ello

decaer no va a ser votada decíamos precisamente eso que valorábamos muy positivamente la decisión de la comisión de salud pública y el consejo interterritorial de haber incluido a estos menores

la actuación del departamento de haber hecho rápido esa actuación y aprovechamos también para una cosa que es para lo que yo he pedido la palabra que sí lo quiero decir que era para agradecer a los profesionales y a las profesionales

en este proceso que se está desarrollando entonces simplemente para que quede nuestra postura

eskerrik asko mahaiburu andrea no se preocupen

de la brevedad voy a repetir un poco lo que ha dicho el señor rico el día once la señora garrido pidió a la señora consejera de salud que vacunaran a los adolescentes de doce a dieciséis años

le contestó lo que ha dicho el señor rico que independientemente de que ya estuviera previsto en el plan de vacunación

el consejo lo aprobó el día quince el consejo de salud pública del estado que ni había oído su interpelación por cierto señora garrido

y hoy veinticuatro de junio ya están vacunados todos los y las adolescentes

ya sabe que les han vacunado salvo es verdad hay

otros niños y niñas acaban de pasar el covid diecinueve y no pueden ser vacunados y otros niños y niñas ya localizados están fuera de la comunidad autónoma y van a esperar a venir

el resto están todos ya vacunados esta moción

nunca porque quien la ha propuesto ya sabía que las vacunaciones se habían producido no por la interpelación que hizo que es lo que ha intentado explicarnos para nada

y fuera del contexto de la moción nos haya dado un mitin chapapote que tampoco aporta absolutamente nada pero sí voy a aprovechar

que en nombre de mi grupo parlamentario felicitamos

su manera humana y eficiente de atendernos eskerrik asko osakidetza eutsi gogor osakidetza eta eutsi gogor sailburu

gracias señora presidenta buenos días señorías los niños son como cemento fresco cualquier cosa que caiga sobre ellos deja huella nuestra moción

en las escuelas memoria respeto y dignidad para todas las víctimas del terrorismo ese es el objetivo último de esta iniciativa presentada por vox ochocientos sesenta y cuatro asesinatos

eta que está terriblemente además ligado a nuestro territorio a nuestra casa esta reflexión no es exclusiva de esta parlamentaria

por eso está ubicado en el país vasco es aquí donde sigue existiendo una parte de población radicalizada que ve con buenos ojos atentados del pasado y es donde más cabe intervenir cualquier rastro de justificación lo cierto es que todos los que hemos sobrevivido el terror de eta y seguimos viviendo aquí o han tenido que irse somos víctimas víctimas porque las bombas mataban a individuos que simbolizaban

era un aviso a navegantes y ha sido el mayor intento de amordazar a la población jamás visto nunca nuestra democracia no es completa no es ejemplar porque lo cierto es que no existe libertad ni para expresar las inquietudes políticas

el amordazamiento al que nos vemos sometidos los que ya tenemos cierta edad es innegable todos recordamos la radio y la televisión dando las tristes noticias de asesinatos las manifestaciones de proetarras que decían a la gente o estás conmigo

alde hemendik he llegado yo a escuchar me han llegado a decir en algunas ocasiones a mí alavesa de toda la vida y a mi presidente santiago abascal alavés de siempre en vox creemos que tenemos que trabajar en los más jóvenes y como ya le dijimos al consejero al señor hay varios programas que están en marcha que son claramente insuficientes o no funcionan lo vimos en la campaña electoral

son los más jóvenes los que se dedican a hostigar a nuestros afiliados los que van a nuestros actos con la única intención de reventarlos

son los cachorros de sortu sus organizaciones juveniles

diferente los jóvenes de ernai se dedican a criminalizar y a amenazar a todo aquel que no les encaja ideológicamente así tenían en durango una pared con el rey de españa ahorcado el mismo que vino el primero de junio a inaugurar

el otro día les daba datos sobre el desconocimiento de los jóvenes españoles en general sobre el terrorismo pero cuál es el conocimiento de los jóvenes vascos yo se lo diré más de la mitad de los universitarios vascos desconocen el atentado de hipercor veintiuno muertos

lo he visto otro dato casi el cincuenta por ciento no saben qué fue ni qué pasó

blanco es decir la mitad de los universitarios y hablamos de gente que ha pasado la selectividad que ha aprobado todas las asignaturas ha desarrollado en teoría todas las competencias clave incluida la social y cívica se imaginan si hacemos esta encuesta con los estudiantes de bachiller

se imaginan si lo hacemos a todos los alumnos matriculados en cuarto de la eso

el gobierno vasco debe hacer autocrítica no funcionan sus modelos no funciona el programa adi adian ni ninguno de los programas como

ni la prevención de la violencia para los jóvenes no ha funcionado porque no se evalúa porque son programas pasivos el alumno no es proactivo utilizan métodos desfasados que no funcionan con los jóvenes

durante más de quince minutos y están diseñando planes obviando lo que dicen los especialistas la visita al memorial

la posibilidad de cambiar eso pues da la oportunidad a los jóvenes de participar de un modo proactivo viendo la historia real del terrorismo sufrido

en vox creemos que el currículum de nuestros jóvenes debería incluir una visita obligatoria al memorial debemos trabajar para que desde el departamento de educación se coordine la posibilidad de que los estudiantes de la eso en especial los de cuarto y también los de fp visiten el memorial

que incluya la fase previa antes de la visita la propia visita y por último evaluación una evaluación que pueda ser en forma de proyecto por ejemplo esta es una metodología de aprendizaje que además ha dado muy buenos resultados

un proyecto en el que participe toda la comunidad educativa las familias los alumnos los profesores pero para eso necesitamos la ayuda del gobierno vasco

ya sabemos que a algunos de ellos les interesa que la historia se olvide lo sabemos y de esta forma conseguir un blanqueamiento de los terroristas desde vox estaremos vigilantes para que esto no ocurra nunca suele ocurrir cuando oímos a gente del gobierno vasco hablar de terrorismo en especial a la gente de gogora

condenan todo tipo de violencia y así logran una división entre derecha e izquierda entre españa

el terrorismo de eta sus consecuencias sociales y políticas no pueden compararse con el terror que haya sembrado ningún otro grupo en españa nada es equiparable al terror institucional que puso en marcha la organización terrorista por eso le repito es una obligación moral para todos nosotros aprobar esta moción que no es otra cosa que el reconocimiento de un museo muy especial

y que como ya les demostré en la interpelación y hoy de nuevo aquí nuestros jóvenes desconocen el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla
y en vox no dejaremos jamás que los verdugos se hagan pasar por víctimas muchas gracias eskerrik asko

el centro nacional para la memoria de las víctimas del terrorismo

en esta ciudad de vitoria tiene como objetivo y así lo pone en sus documentos preservar

que encarnan las víctimas del terrorismo construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa

y de los derechos humanos y contra el terrorismo este museo abarca

que ha padecido españa desde junio de mil novecientos sesenta fecha del asesinato de la niña begoña urroz

hasta hoy comprende el terror de eta la guerra sucia

los anarquistas y el frap constituye por lo tanto un recurso didáctico que tenemos a mano de primer orden del que antes no disponíamos y nos parece que es una oportunidad que tenemos que aprovechar para formar a nuestros jóvenes en uno de los temas más importantes el conocimiento de primera mano de la historia reciente de euskadi y sobre todo la deslegitimización de la violencia

sin prejuicios es una propuesta que en realidad no va contra nadie

y el odio que deberían de ser enemigos comunes de todos los que nos sentamos en esta cámara

a favor de un futuro mejor el futuro que representan nuestros jóvenes los cuales afortunadamente no tienen en su memoria grabada las terribles imágenes

no podremos olvidar pero precisamente por eso deben conocer a fondo lo que ha pasado aquí

necesitan aprender lo que pasó entenderlo bien e inmunizarse para siempre contra ello

el derecho a conocer de la manera más directa y objetiva posible algo tan terrible que ha marcado la vida de euskadi hace todavía tan poco tiempo y que duró tantos años tienen derecho a saber

porque tienen la responsabilidad de evitar que vuelva a ocurrir y este objetivo el de enseñarles de forma honrada lo que ocurrió es una obligación intergeneracional que no puede ser discrecional de los centros educativos entre otras razones

muy intensa que están transmitiendo a los jóvenes una versión atenuada justificada y distorsionada de lo que pasó

la violencia en toda la sociedad y en todas sus manifestaciones

este fenómeno porque forma parte de lo peor de nuestra cultura y de nuestra vida todavía hoy nos parece normal

dosis de violencia inaceptable es que influyen en la personalidad y en la conducta de las generaciones futuras y así nos va solo desde el pasado día diecisiete de mayo por ejemplo han sido asesinadas por violencia de género diecisiete mujeres en nuestro país

la violencia contra las mujeres y los delitos de odio

casi un ciento treinta por ciento más que el año anterior un incremento muy significativo de los que el diez por ciento de los cuales

la ideología política según la ertzaintza a los autores de todos estos delitos

mantener la coherencia mental si hubieran visitado a tiempo el centro memorial de las víctimas del terrorismo

esto de la violencia no es una cuestión del pasado de ese pasado que algunos quieren olvidar demasiado deprisa porque no les gusta el espejo

es algo tan reciente y tan presente en nuestra vida diaria que como todos sabemos hace muy pocos días el exconcejal del partido popular iñaki garcía calvo y tres de sus acompañantes sufrieron en esta misma ciudad muy cerca de aquí un ataque

preguntaron a garcía calvo previamente si pertenecía al partido popular

justifica la violencia qué educación han recibido estos jóvenes no hay acaso responsabilidad de ello por parte de sus padres o de sus centros educativos qué les estamos transmitiendo y sobre todo qué no les estamos transmitiendo la violencia y su justificación siguen tan vivas hoy que en este mismo parlamento

lo que toda la sociedad vasca les está reclamando ya hace décadas que digan de una vez por ética por lógica por coherencia y por honradez que la violencia

ni por motivos políticos ni por ningún otro que fue una salvajada propia de seres irracionales y enfermos y que se comprometen a que nunca más vuelva a ocurrir

por eso son tan importantes estas visitas al centro memorial de las víctimas del terrorismo yo creo que en otros lugares de europa esta cuestión no tendría ni debate posible porque no podemos construir una ciudad

sobre cimientos huecos porque rechazar y condenar la violencia es un mínimo ético exigible a cualquier persona

entonces nos estamos jugando el futuro muchas gracias eskerrik asko gil jauna erantzunen txandan

buenos días tal y como se recoge en la ley de víctimas del terrorismo en la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas aprobada por este parlamento

el reconocimiento y reparación a todas las víctimas del terrorismo y especialmente desarrollar una política de memoria que tiene como objetivo dejar claro que nunca hubo ni hay ni habrá justificación para la actividad terrorista que la memoria ha de contribuir al asentamiento de la convivencia de la paz y la libertad y por tanto a la deslegitimación

a la memoria tiene que tener como objetivo fundamental deslegitimar el terrorismo y reforzar el estado de derecho y la convivencia integradora de toda la ciudadanía que la memoria tiene que ser una herramienta fundamental para la deslegitimación ética política y social del terrorismo esta ley la ley de víctimas del terrorismo la ley de reparación

y la ley que da lugar a la constitución del memorial fueron puestos en marcha por un gobierno socialista en madrid y un gobierno socialista en euskadi en aquel momento en el congreso de los diputados se aprobó la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo

se crearía el centro nacional de reconocimiento y memoria a las víctimas del terrorismo a todas las víctimas incluidas en esa ley a las víctimas de eta a las víctimas del gal del batallón vasco español a todas aquellas que están incluidas en esa ley a partir de ahí desde el gobierno vasco entendiendo que este era un instrumento más para la política de memoria impulsamos con el gobierno de españa un protocolo de colaboración para que ese centro tal y como se establecía en la ley fuera realidad lo antes posible en euskadi porque así se establecía en dicha ley desde que los socialistas

ninguna noticia hubo respecto al avance de este proyecto tan importante para asentar la memoria y la convivencia y también para que fuera un lugar de homenaje y recuerdo permanente a las víctimas del terrorismo no tuvimos ninguna información

y la respuesta que se nos dio es que no había ninguna noticia por parte del gobierno de españa para el impulso de ese proyecto tan importante estamos hablando

y dos mil trece estábamos sorprendidos no entendíamos que un gobierno con el apoyo de un partido que tanto habla de las víctimas del terrorismo

que tendría que empezar a ser ya en aquel momento en el año dos mil trece una realidad en euskadi hay que recordar que la creación y puesta en marcha del centro nacional para la memoria de las víctimas es un acto de decencia democrática

de civismo de compromiso social y respeto a la ley y representan los principios y valores de cualquier sociedad democrática si el olvido es una forma de infidelidad a la memoria

para ello el terrorista suele usar interpretaciones del hecho que en realidad hacen desaparecer a la víctima como víctima porque se lo tendría merecido y por lo tanto habría sido una cuestión

porque las sociedades suelen tener una tendencia autodefensiva a pasar las páginas muy deprisa a tal fin el gobierno vasco se ha ido dotando de una serie de instrumentos

entre ellos podemos citar el acuerdo gizalegez conformado por cuatro bases de educación para la convivencia el plan udaberri dos mil veinticuatro que nace para contribuir

a través del pleno ejercicio de los derechos humanos el programa elkarrekin y el programa adi adian que en su momento los socialistas en el gobierno vasco denominábamos programa de víctimas educadoras y que ha tenido un recorrido positivo en los centros escolares todo un compendio de instrumentos puestos al servicio de la comunidad educativa para reforzar las políticas de memoria y convivencia

de todos los centros educativos de euskadi no con el ánimo de imponer sino de facilitar las herramientas necesarias para avanzar en políticas de memoria

imponer un determinado recorrido de visitas a uno de los centros en este caso el memorial de víctimas los estudiantes de euskadi podrán ir y sería bueno que lo hiciesen

como también lo podrán hacer al instituto de la memoria gogora o al museo

ese es nuestro criterio y por eso no apoyaremos su moción en esta ocasión

tanto hoy como en el día de la interpelación pero vuelvo a decir estos planes no funcionan por lo cual cuando algo no funciona vamos a cambiarlo y a mejorarlo si está dentro de nuestras capacidades

a que los alumnos visiten el memorial al margen del resto de planes que estén ya efectuados

no debatimos con vox porque viene a crispar ahora expliquen ustedes eso es vergonzoso el espectáculo que ofrece la mayoría de los grupos de esta cámara rechazando

haciendo gala de su carencia del más mínimo talante democrático hablan de acoger al diferente de lucha contra la discriminación de igualdad llegan hasta a hablar de respeto es indecente hoy el pnv el partido que recogía las nueces del árbol que meneaba

e insiste en su apuesta por la perversión de la historia y si les dejamos logrará que en pocos años el terrorismo parezca una alucinación exclusiva de las víctimas

eta nada novedoso se puede decir se manifestaron airados cuando fue inaugurado el memorial de las víctimas del terrorismo porque no les interesan los reflejos que reflejan su verdad su estrecha relación con la violencia y hoy les imagino encantados al saber que no están solos en su pelea

de podemos su próximo bocado y no quiero olvidar a quienes siguen estos debates desde la sala de prensa quienes dan por bueno lo que aquí está sucediendo este burdo e impresentable intento de silenciar a quien representa a una parte de esta sociedad

vasquista la primera vez fue noticia y mereció críticas a los protagonistas la segunda dejó de serlo

sin los medios este cordón antidemocrático no sería posible diferentes cotas de responsabilidad responsabilidad de todos una vergüenza una prueba de que este parlamento ni es la casa de la palabra democrático y como me sobra tiempo y el tiempo es mío quiero trasladarles la lectura de un texto que está en el memorial por cierto recomiendo su visita a todos los que no hayan ido

es de una de las fundadoras de la asociación víctimas del terrorismo se llama ana maría vidal abarca viuda del asesinado por eta jesús ignacio velasco zuazola asesinado a sus cuarenta y siete

jefe de los miñones de álava que dejó cuatro niñas huérfanas una de esas niñas ana velasco es una gran amiga mía a la que admiro

viuda por la vileza de unos asesinos sin corazón ni conciencia y encima cobardes decía ganas siempre

ganas siempre cuando procuras no hacer daño a nadie ganas siempre cuando defiendes la vida

yo con ellas me quedo y muchas gracias por nada y por manifestar otro día más su educación y su decoro parlamentario eskerrik asko

gracias señora presidenta nada muy brevemente para decir que

en el que muy probablemente va a salir rechazada esta propuesta es una propuesta

contra la violencia yo solamente quiero aprovechar para hacer tres cosas una

a todos los centros educativos a organizar visitas

repito que es un recurso una oportunidad única una oportunidad fantástica sobre un tema fundamental

segundo quiero aprovechar para hacer un recordatorio de las víctimas del terrorismo y para agradecer a sus asociaciones

y las lecciones que nos han dejado de democracia y de valentía y en tercer lugar quiero también aprovechar para agradecer desde aquí

y al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado el trabajo que hacen cada día combatiendo la violencia en euskadi gracias eskerrik asko

del partido socialista del partido más antiguo de españa y más antiguo de euskadi del partido que tiene una larga historia de

nosotros sufrimos en primera persona junto con otros partidos de izquierda el levantamiento franquista del general franco la guerra civil y las represalias posteriores

fusilamientos entierros en cunetas de las que todavía no se conocen muchos de los nombres

después hicimos la transición y la hicimos con toda la generosidad del mundo

cárcel y represión fueron generosos y facilitaron la puesta en marcha de la democracia que ahora

solución de continuidad empezábamos a sufrir ya

en el país vasco acoso que sufrimos también los socialistas en primera persona persecuciones denuncias represalias

a pesar de todo supimos ser generosos e inteligentes pusimos en marcha con un gobierno socialista otra vez con zapatero de presidente rubalcaba de ministro del interior

lehendakari de euskadi poner en marcha un proceso de diálogo y de firmeza con eta que consiguió hacer acallar a eta y saben lo que oíamos entonces que traicionábamos a los muertos que no entendíamos la memoria

que estábamos rompiendo españa le suena porque eso se vuelve a decir ahora por parte de ustedes de la derecha y de la extrema derecha en relación con los indultos lo mismo exactamente lo mismo porque ustedes dicen querer a españa pero no la quieren porque para querer a españa hay que querer a los españoles y esa parte

a ustedes de todas formas nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir una sociedad mejor como lo hicimos en la república como lo hicimos

haciendo ahora y ahora vamos a seguir empeñados en poner en marcha la reparación la memoria y la justicia que merecen las víctimas del terrorismo pero también estamos dispuestos y lo va a poner en marcha el consejo de gobierno que es una proposición de ley de memoria democrática porque también hay que tener justicia con aquellos españoles que lucharon por la libertad que han sido olvidados

porque me gustaría mucho a mí que ustedes desde vox fueran capaces de aprobar lo veremos pronto en el congreso de los diputados una ley de memoria democrática y no se dediquen a poner obstáculos como hicieron junto con gente del pp

depositado en un mausoleo rodeado de miles de sus víctimas

absolutamente nefasto que se sacará al dictador del valle bueno pues cuando uno defiende la democracia la democracia se defiende en todos los ámbitos

tengo amnesia creo que esa es la diferencia entre ustedes y nosotros eskerrik asko pastor jauna eztabaida amaitu da eta

hizo una interpelación que se titulaba en relación con el fuerte incremento del precio de la electricidad y las medidas tomadas por el gobierno vasco

se titulaba y dos de las tres propuestas de la moción se referían a posibles actuaciones que debieran de llevarse adelante a través del gobierno vasco pero había una tercera

y claro como ya se ha bajado el iva de la electricidad parece que se ha desactivado toda la moción

que una vez más se está utilizando este parlamento para hacer política madrileña con el objetivo de desgastar al gobierno de madrid ustedes verán es una pena porque era un debate también muy interesante para aquí gure proposamenera itzulita

la acción climática es una obligación ética con las futuras generaciones

sigue sin ser adecuado y que las actuaciones puestas en marcha no coinciden con los objetivos que nos hemos puesto

lanzaba avisos decía que euskadi cuenta con un elevado porcentaje de empresas y empleos en sectores en riesgo de transición y nos decía también que el pacto

el ipcc sacaba un avance del séptimo informe de evaluación que se publicará

pero cuyas principales conclusiones ya están establecidas y las conclusiones dan

nos dicen que cualquiera que sea el ritmo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero los impactos devastadores del calentamiento en la naturaleza y la humanidad se aceleran

que ganemos importa nos dicen también y nos afecta que casi todas las zonas costeras podrían ser golpeadas por tres o cuatro catástrofes meteorológicas simultáneas o más olas de calor sequías ciclones incendios inundaciones enfermedades etcétera y que además hay que tener en cuenta los efectos de otras actividades humanas perjudiciales para el planeta

contaminación propagación de enfermedades etcétera y concluyen el mundo se enfrenta a retos entrelazados y complejos y nos da un aviso serio

puede recuperarse de un cambio climático importante al evolucionar a nuevas especies y crear nuevos ecosistemas pero la humanidad no puede así que esto no va de salvar el planeta sino en todo caso de salvarnos a nosotros y a nosotras mismas y nos dicen también

pero una sola acción puede tener efectos en cascada positivos así que la acción positiva que podamos hacer hoy esperamos que tenga también efectos cascada dictamina el ipcc que necesitamos

en todos los niveles los individuos las comunidades empresas instituciones y gobierno tenemos que redefinir nuestra forma de vida y de consumo

erkidego honek erantzukizunak ditu si observamos nuestro aparato productivo desde un punto de vista material

un enorme aparato digestor de todo tipo de materiales que introduce

de los que el setenta por ciento son importados los digiere creando productos y servicios exporta la mitad de lo que produce consume el quince por ciento de lo que produce y excreta por el camino

muchos millónes de toneladas de residuos veinticinco en concreto entre los sólidos los líquidos y los gaseosos entre ellos el que es

el ce o dos que supera con creces cualquier otro producto producido en esta parte del país en concreto según los últimos datos de ihobe dieciocho

si el objetivo es la descarbonización y nuestra principal producción nuestro principal producto es el ce o dos tenemos un problema evidente evidente

o no del todo las mejoras en intensidad de carbono

hablar de que las mejoras en eficiencia hacen que la riqueza medida en dinero no ha conllevado un aumento de las emisiones y es cierto la economía

que el hecho de que hubiera mejoras en la eficiencia de los procesos productivos no se traducía en una reducción del uso de recursos sino que la productividad

era utilizada para producir más con lo que el uso material de un determinado producto no descendía sino que aumentaba por eso por eso es tan difícil pensar

sea posible alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático

la reducción de emisiones ha sido testimonial y estamos en un momento histórico en el que no solo importa la intensidad de carbono sino también la emisión absoluta y real de cada sector porque las moléculas de carbono no entienden de productividad

y esa acumulación sigue inexorablemente en aumento incluso en tiempos de pandemia ze pandemiak irakaspen batzuk utzi dizkigu asko hitz egin da zoonosiaz

nuestras políticas y se juzgarán como buenas o malas políticas según lo que hayamos hecho en este campo

la iniciativa de hoy tenga buena consideración pero sobre todo que salgan unos buenos trabajos de los compromisos que tomamos hoy eskerrik asko

bueno egun on guztioi efectivamente estamos ante

importante básicamente porque por lo general en las cuestiones que tienen que ver con la transición energética pues las fuerzas políticas o los grupos que sostienen al gobierno y algunos de los que formamos parte de la oposición tenemos visiones

llegar a lugares comunes pero en cualquier caso creo que hay ciertos denominadores comunes en la transacción que son relevantes y que requieren ser mencionados también voy a utilizar mi tiempo para plantear algunas dudas en cualquier caso que tenemos con algunas de las referencias

con la literalidad del texto dudas respecto a lo que pueda acontecer respecto a ellas valga la redundancia en primer lugar creemos que

es oportuno y es acertado y en ese sentido creíamos que era necesario que nos sumáramos

de aprobar una ley de cambio climático a la mayor brevedad sí que es cierto que en lo que se refiere a nuestra enmienda a la totalidad inicial planteábamos un marco temporal

que sea a la mayor brevedad entendemos que los grupos que sostienen al gobierno y el propio gobierno sabe de la emergencia climática porque así fue declarada aquí y por tanto de la necesidad de que los tiempos

cursar y tramitar la ley de cambio climático luego sí se menciona en el tercer punto la necesidad de volver a activar el grupo de expertos

cuestiones que nosotros reflejamos en nuestra enmienda además de tratar lo que tiene que ver con el pacto vasco de la energía también trate lo que tiene que ver con la nueva ley de cambio climático nueva no la primera ley de cambio climático de euskadi

en fin nos da un cierto miedo que la legislatura anterior el comité de expertos que se formó fue plural fue a propuesta de cada uno de los grupos parlamentarios con

dos por cada grupo parlamentario en este sentido el enriquecimiento que podía aportar ese comité de expertos a lo que tenía que ver con el contenido del pacto vasco de la energía desde luego

consensos a nuestro entender o desde luego sí en el fruto del debate iba a plantear encima de la mesa las diferentes visiones y perspectivas que hubiese desde los diferentes expertos y desde sus propias

ahora tal y como está redactado en el sentido de que este comité de expertos será a propuesta del gobierno vasco y en su caso también validado por el parlamento vasco

de si tendrá ese grado de pluralidad que en su momento lo tuvo esperemos que desde luego sí sea así porque será para bien del conjunto de la sociedad y luego por otro lado

que el ente vasco va a gestionar o en principio se le va a encomendar

al comité de expertos y digo que tenemos dudas porque la legislatura anterior a razón de la misma cuestión esta secretaría técnica del eve finalmente fue subcontratada es decir se hizo un proceso de licitación que no terminó de

pública de medio millón de euros en la que además se presentaron ciertas consultoras que

y demás no se adjudicó ya digo porque finalmente acabó la legislatura pero miedo nos da que

las funciones de la secretaría técnica que debiese hacer el ente vasco de la energía se subcontrate otra vez en este sentido esperemos que no sea así queríamos poner

encima de la mesa porque creemos que en un ámbito tan relevante y tan importante como este

a consultoras de estas características que además tienen intereses encontrados

con la ponencia nos parece una buena noticia que se articule una ponencia sobre la descarbonización

el señor otero porque es necesidad imperiosa que aceleremos la descarbonización en nuestro país teniendo en cuenta las tasas

en el marco de la ponencia bienvenido sea en cualquier caso ya digo que para nuestro grupo parlamentario resulta del todo prioritario que en el marco de la ley de cambio climático sea ahí donde se establezcan los porcentajes y los compromisos de plazos

tal y como ha sido así en la ley de cambio climático a nivel estatal pese a que el porcentaje que figura en la ley estatal sea menor del que nos hubiese gustado pero la aritmética

en euskadi haya un compromiso mayor en lo que respecta al porcentaje de descarbonización

una buena noticia que se incluya en esta transaccional

podamos aportar y podamos plantear nuestras opiniones o nuestras posiciones respecto a la cuestión y en este sentido y por concluir porque

una buena noticia creemos que en esta cuestión en concreto que es uno de los mayores retos y no el mayor reto que tiene la sociedad y las administraciones públicas y del tejido productivo haya acuerdos y se planteen certezas a la ciudadanía ya digo

hemos querido ejercer la responsabilidad necesaria para sumarnos a este acuerdo de una mayoría amplia del parlamento vasco porque creemos que es de justicia y de necesidad

realmente se traduzcan en acuerdos materializables que no solo sean articular determinados mecanismos de compartir

no sea positivo y en la línea en la que nosotros creemos que se debe ir en la descarbonización y también en la articulación de una nueva ley

buenos días al trabajar este punto del día miren yo

la creación de la comisión de personas expertas en energía y de verdad

porque realmente no esclareció la necesidad de la creación de dicha comisión

me pareció más una querencia de bildu de liderar todo lo que tenga que ver las iniciativas con el cuidado del medio ambiente ojo que muy bien eh

a favor pero sí que es cierto que vemos la necesidad de que haya

que tomamos y en la propia exposición de motivos de la pnl que se presenta hoy aquí ya dice que la comisión se creó

número de reuniones y que lo que realmente no terminó de hacer fue la encomendación al eve el ente vasco de la energía de la licitación de los contratos

o sea que lo que deviene de una comisión que tiene que trabajar para asesorar en la descarbonización en ir hacia adelante para combatir el cambio climático sirve para devolverle la pelota al gobierno entonces a nosotros

que la comisión va a fijar objetivos pero no es así porque los objetivos ya están fijados si me dicen que la comisión está orientada

sería favorable a nosotros lo que nos gustaría es que la comisión sirviera para centrar el tiro y tener en cuenta la propuesta de la comisión europea

un paquete de invierno energía limpia para todos los europeos sobre la ordenanza de la transición energética

en mi enmienda principios básicos de modelos de gobernanza de la transición energética relato propio que sea claro y didáctico en el que se expliquen las transformaciones que la transición va a suponer

la edificación y los impactos que esto puede tener en la economía y el empleo

el impacto territorial y social que sea inclusiva y participativa

de la sociedad la estrategia para la descarbonización su elaboración y su seguimiento deben estar abiertos a los diferentes sectores económicos

tiene que ir de manera transversal a toda la sociedad porque todos nos vamos a ver influenciados

tiene que ver con el cambio de consumos con el cambio de hábitos tiene que ver con los autónomos tiene que ver con las pymes tiene que ser justa y equitativa que no deje a nadie atrás en el camino para conseguir los objetivos es importante estábamos hace unos plenos hablando

diseñar la descarbonización va a influir en que algunas personas se vean

tiene que ser eficaz y eficiente de acuerdo con los compromisos internacionales a los que nosotros nos hemos comprometido en cuanto a energía y cambio climático que cuente con instrumentos objetivos cuantitativos a cumplir y herramientas de desarrollo de cuantificación e inversiones y plazos importante las inversiones y los plazos procedimientos

para valorar los resultados y nos va a permitir analizar

es que señorías ya sabemos que se va a crear la comisión ya he visto la transacción

pero por favor para que sirva para algo más que para que el eve contrate

colaboración en esa comisión

todas las sensibilidades con respecto a cambio climático a descarbonización a energías a sectores económicos y a sectores sociales que puedan verse

influenciados por lo que nosotros vayamos a decidir y miren al final de cuentas lo que tenemos que ser es realmente útiles

perdamos en el gigante de la administración seamos capaces de llegar al ciudadano al empresario al autónomo y por eso estamos aquí para mejorar la calidad de vida de los vascos de manera eficaz no sé si crear una ponencia alargar en el tiempo la toma de decisiones pueden ser que redunde en la calidad de vida a corto plazo

lo que nos da miedo es que este tipo de cosas se alarguen en el tiempo yo anuncio que

pero no porque estemos en contra de que se haga una valoración de cómo tenemos que acompañar

o la descarbonización sino por los pelillos que nos vamos dejando los hilillos que nos estamos dejando en el camino para llegar a acuerdos porque

esta cámara pueda tener opinión en cómo hacer las cosas

de trazar una hoja de ruta con los siguientes pasos que vamos a tener que dar como sociedad no solamente el gobierno no solamente

de cara a la tan necesaria transición energética hacia nuevos modelos sostenibles y neutros en emisiones de ce o dos un tema que solo tiene sentido un debate que solo tiene sentido si somos capaces de traerlo como lo hemos traído

y es por eso por lo que quiero comenzar mi intervención dando las gracias por el esfuerzo y la generosidad de los diferentes grupos que han trabajado a lo largo de estos días para lograr la transaccional que vamos a pasar a votación hoy aquí

en segundo lugar al señor grajales de nacionalistas vascos

de elkarrekin podemos izquierda unida por haber trabajado y haber logrado una transaccional que yo creo que da coherencia hoy tenemos que ser capaces de dibujar en esta pantalla que tenemos detrás de nosotros dentro de unos escasos minutos

hoy tenemos que ser capaces lo he dicho en alguna ocasión con diferentes temas

y dejar en un cajón aunque sea por un rato por esta media hora de debate de dejar en un cajón aquello que nos separa lo decía el señor otero en su intervención

sobre hidrocarburos sobre gas hemos discutido sobre

eólicos seguiremos discutiendo me imagino que tendremos tiempo de discutir

sobre corredores energéticos su necesidad o no necesidad pero desde luego hoy es el momento de hacer visible de hacer visible un gran consenso en relación

más que el reflejo de una sociedad democráticamente sana donde

del uniformismo y de la uniformidad quiero ser breve y llevo mucho tiempo debatiendo esta semana sobre si incluir o no incluir datos había dos factores a mi favor para eliminarlos de mi intervención por un lado saber que el señor otero iba a hacer el despliegue previo

es de agradecérselo señor otero porque la verdad es que nos facilita la vida a los que hablamos después de usted

por la lectura del diario de sesiones del pleno del día catorce de marzo del dos mil diecinueve donde de alguna forma se comenzó con la iniciativa con una propuesta no de ley también de mano de eh bildu del señor otero

de verdad quienes estén siguiendo con interés el debate que estamos manteniendo

de aquellas intervenciones a leer el diario de sesiones porque la fotografía el esquema yo creo que quedó bastante claro en aquel momento

desgraciadamente aquello que se dijo allí y los datos globales que se dijeron allí o siguen siendo los mismos

sin embargo desde aquella hasta ahora no podemos decir

que hayamos estado parados es verdad que en este tiempo

que podríamos incluso considerar históricos y que yo creo que es necesario poner sobre la mesa en primer lugar

el gobierno vasco declara la emergencia climática y ambiental

como objetivo central de nuestro país en segundo lugar

de la gran oportunidad que fue la aprobación en el congreso de los diputados de la ley siete barra dos mil veintiuno de cambio climático y transición energética

por la ministra socialista teresa rivera pero que logró agrupar junto al voto socialista una amplia mayoría parlamentaria como la que hoy espero podamos lograr alcanzar en esta cámara sí es verdad que hay un dato que me resisto a compartir con sus señorías

de este dos mil veintiuno y lo ha realizado el gabinete de prospección sociológica del gobierno vasco

cuatro años ha incrementado en un cuarenta y cuatro por ciento el número de personas que consideran el cambio climático como una amenaza global como una verdadera catástrofe medioambiental pero es que más allá más allá en ese mismo período en esos últimos cuatro años un treinta por ciento de ciudadanos y ciudadanas

cuando se habla de este tema es una fotografía de la preocupación de la sociedad vasca y que justifica de alguna forma que estemos constantemente trayendo a esta cámara los debates sobre el cambio climático y sobre la transición

es verdad que en general la sociedad vasca percibe este reto como algo colectivo como algo a lo que nos tenemos que enfrentar

y mundo social en su conjunto pero también es verdad y ese dato yo creo que es importante que lo compartamos aquí que se ponga sobre la mesa en este parlamento cada vez es mayor

que comienza a mirar a sus instituciones en busca de respuestas ante esa sensación de miedo impotencia amenaza y preocupación desde luego no podemos fallarles hoy

ya lo ha hecho pero bueno es verdad que lo que vamos es a reafirmar los objetivos establecidos en la iniciativa

que el agotamiento de los recursos energéticos fósiles y el cambio climático se encuentran entre las principales amenazas para nuestro bienestar y para un futuro justo y sostenible

públicas con el objetivo de superar el uso de recursos fósiles

ratificamos también que en este proceso que no tiene marcha atrás resulte imprescindible articular un debate amplio sobre la transición energética más allá

un procedimiento para poder aprobar a la mayor brevedad posible una ley vasca de cambio climático y transición energética así como la ponencia y grupos de las que ya han hablado quienes me anteceden y por tanto no voy a insistir en la cuestión lo he dicho en más de una ocasión estamos en un momento vital cada día que dejemos pasar sin hacer nada es un día que echaremos de menos dentro de unos años es obligación de este parlamento el poner el debate sobre el cambio climático y la transición energética

de nuestras prioridades seamos ejemplo mandemos a la sociedad el mensaje que están esperando de nosotros y nosotras digámosles que nos preocupa nos ocupa

hoy la cuestión es que a poco más de dos años desde que aprobáramos la ley de sostenibilidad que pasó de ser de las administraciones públicas a serlo de euskadi gracias a un amplio acuerdo político de ponernos de acuerdo en el camino a seguir en lo que llamamos el pacto vasco de la energía volvemos a estar ante un amplio acuerdo para afrontar la transición energética

hacia un nuevo modelo energético precisa de amplios consensos políticos para que pueda materializarse hori dela eta trantsizio energetikoari buruzko

a través de acuerdos interinstitucionales y sociales que garanticen llegar a consensos en este área en este proceso que ya es irreversible

y hoy estamos dando un paso importante en esta dirección la futura ley de transición energética y cambio climático tendrá que analizar las posibles proposiciones para la política energética

las alternativas existentes su coste económico así como los objetivos estratégicos necesarios para poder alcanzarlos de la manera más eficiente posible garantizando la competitividad económica la seguridad del suministro el crecimiento económico la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental y como siempre

hacia esta transición para poder adquirir un verdadero compromiso social es preciso minimizar los perjuicios que puedan sufrir los colectivos más vulnerables de la sociedad

de este modo se conseguirá que la transición sea justa y fomente la cohesión económica e interterritorial también pensamos que la transición energética inevitablemente producirá cambios en el tejido productivo y por ello debemos considerarla como una oportunidad de desarrollo para este país esta transición energética

para que la industria vasca mantenga su liderazgo en desarrollo tecnológico en innovación

de los cambios estamos dando un paso fundamental para la transición hacia un nuevo modelo energético que como país debemos encarar sin demoras hace cuatro años que venimos hablando de la necesidad de construir un pacto en torno a la energía y estoy convencido de que hoy damos un nuevo paso

hacia esa transición al nuevo modelo energético porque la lucha contra el cambio climático como ya se ha dicho aquí es una de las principales motivaciones para actuar en el área de la sostenibilidad energética

también en ámbitos como el de la producción de la distribución de los precios etcétera esta transición requerirá actuaciones que permitan cambiar patrones y modos de consumo

la energía de origen renovable este cambio puede y debe producirse mientras se mantiene un cauce razonable de energía para los usuarios y se garantiza en todo momento la seguridad del suministro tanto a particulares como empresas

y si somos capaces de apuntalar desde la diferencia un acuerdo interinstitucional y social la ejecución de los acuerdos en la buena dirección está garantizada

la mayor aportación a los primeros tres puntos que fueron nuestra enmienda a la totalidad que es la de poner en marcha una ponencia como decía el señor otero un ejercicio de inteligencia colectiva como dirían nuestros clásicos

de cara a que ese acuerdo social sea una realidad legea bera herri akordio horren funtsezko oinarrietako bat da guretzat

larrea que tiene un poco la sensación de que

todo este acuerdo todo lo que se propone el acuerdo de alguna manera devuelve la pelota o los trabajos que devuelve la pelota al tejado del gobierno y sí sí sí claro

un informe desde la ponencia u otro informe desde la comisión de expertos o todo lo que salga de aquí al final va a dejar las no sé cómo decir las cuestiones o las recomendaciones

hoy rompo una lanza a favor de los grupos que sostienen al gobierno y el gobierno en este sentido porque todo lo que llevamos de legislatura diciendo o quejándonos

yo no sé cómo va a terminar esto pero el gobierno tiene por delante el plan de residuos

climático la ley de movilidad la ley de transición energética

etcétera no y yo lo que digo es que yo valoro muy positivamente que se abra a la reflexión cuando podía no hacerlo porque

la propia creación de la ponencia yo la valoro en positivo desde ese lado

pues precisamente estos son unos mecanismos unos cauces de participación cuando nosotros hablamos de activar la inteligencia colectiva de este país ante los retos importantes que tenemos de cara al futuro estamos hablando

para que puedan hacer una aportación cualitativa en ese grupo de expertos

de asesoramiento externo también al gobierno que puede influir en las políticas climático energéticas etcétera o vamos a tener todos la posibilidad

traer diferentes sectores de la sociedad que van a estar o que deben estar implicados en exponer sus quejas sus problemas o sus orientaciones de cara a las planificaciones que se tienen que hacer y después claro sí

de la cámara y del gobierno es la que es y al final el gobierno tendrá una responsabilidad unas decisiones que tomar incidiremos intentaremos

hasta lo más lejos posible para poder influenciar

sean aquellas que se parezcan a las que usted decía y que ustedes han puesto

en su enmienda pero no es solo decir eso sí es dejar la pelota

pedimos una implicación de los partidos en ponencia en la comisión de expertos y

para que esto sea lo más consensuado posible o por lo menos podamos dar voz a la mayor

es que es muy difícil que va a ser muy difícil está siendo de hecho ya muy difícil en todos los lados en la anterior comisión de expertos el partido socialista designó para nuestra comisión de expertos a natalia fabra entre otras personas

en el senado porque también hay una ponencia de descarbonización y para mí dijo unas frases que son completamente

este proceso y las quiero leer textuales decía ella que corremos el riesgo

a sus impactos distributivos y porque no nos podemos permitir que fracase tenemos que asegurar que los costes y los beneficios de la transición ecológica se reparten de forma equitativa en la sociedad

no generen desequilibrios distributivos y allí donde sea inevitable que las políticas de lucha contra el cambio climático generen ganadores y perdedores será necesario introducir mecanismos de compensación

por medidas una protesta a medidas que tenían que ver con la transición ecológica la rebelión en chile empezó también con la subida del precio del transporte que está relacionada con

los partidos que lo promovieron que fueron todos menos la extrema derecha en suiza se perdió también atendiendo a cuestiones energético climáticas van a ser medidas complicadas y difíciles y va a haber sectores perdedores y ganadores más nos vale hacer una

unos planes lo más abiertos lo más participados posibles

esta iniciativa lo que pretende es precisamente eso que estos planes involucren en lo máximo posible a la sociedad
que nos rodea ese es el espíritu y no hay más eskerrik asko otero jauna

zurea da hitza larrea andrea favorablemente lo que usted acaba de decir

tengan claro que nosotros vamos a participar y vamos a colaborar y desde nuestro punto de vista vamos a intentar llegar a ese consenso altamente respaldado

compren también el hecho de que necesitamos luchar contra el cambio climático pero le vuelvo a decir que nos abstendremos en la transacción que ustedes han firmado porque tenemos

siempre es bueno que podamos llegar todos a acuerdos

esas reticencias que o esas dudas sobre el posible que se desarrolle bien